lan esparru honetan esta misma semana el lehendakari ha reiterado la firme apuesta del gobierno por la empresa vasca como cauce para garantizar la reactivación económica y la creación de empleo

a la administración pública le corresponde facilitar las condiciones y aplicar medidas de estímulo para que la empresa invierta crezca y genere

es la falta de financiación por ello señor consejero quisiéramos saber qué actuaciones ha puesto en marcha este año dos mil catorce el gobierno vasco

horren aurrean zer egin behar dugun pues ante esa coyuntura el gobierno lo que tiene que hacer y lo que ha hecho este año impulsar dentro de la estrategia para la reactivación de la economía y el empleo en uno de sus vectores principales un conjunto de medidas un paquete de medidas financieras dirigida

la financiación a las empresas porque las empresas suponen el noventa y nueve por ciento de nuestro tejido económico estas empresas pequeñas medianas autónomos y profesionales de qué manera pues a través de dos vías fundamentalmente señoría una vía en virtud de la cual se pone en marcha un programa de apoyo financiero a la renovación de deuda a la adecuación de deuda de corto a medio y a largo plazo y aderezado con un programa de financiación también de la inversión en colaboración con dos tipos de entidades financieras cajas y bancos y sociedad de garantía recíproca de manera que el riesgo

el prestamista respecto al prestatario quede cubierto a través

para el buen fin de la operación son prestamos a tres cinco siete años en condiciones de mercado en este momento muy beneficiosas ganamos setenta puntos básicos en el diferencial respecto al programa del año pasado tanto en lo que hace referencia al diferencial general como al indicador del euribor en este momento eso supone que sea una financiación setenta puntos básicos inferior

del año anterior juntamente con ello se va a poder ver que se tiene una financiación para ese tipo de actuaciones que he dicho

para empresarios individuales y autónomos y complementariamente a ello este año

el gobierno también ha puesto en marcha dos fondos financieros importantes uno dirigido a la toma de participación y a la financiación mediante créditos participativos en el sector industrial vasco y otro dirigido a la mejora

de los trabajadores en las empresas en las que ellos son trabajadores en el mundo de la economía social y juntamente con ello en otros en tercer ámbito y es el que apoyemos proyectos de emprendizaje en actuaciones innovadores de la economía vasca fundamentalmente en el ámbito de la industria y de las telecomunicaciones son dos bloques de medidas financieras que a lo largo del mes de enero y del mes de febrero que el gobierno ha puesto en marcha enmarcadas

marco de recuperación económica y promoción del empleo
dotando de financiación a empresas vascas eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

según datos ofrecidos por salaketa en los últimos años treinta y cinco vascos han muerto en prisión en lo que va de año son ya tres víctimas mortales de esta política penitenciaria

uno guipuzcoano en la cárcel de burgos uno más el preso elorriotarra arkaitz bellón blanco

tres agresiones por parte de funcionarios de prisiones orain dela gutxi

horren arrazoia kartzela eskuduntzaren ukazioa pensamos que hay alternativas al régimen cerrado que se aplica por sistema pensamos que hay posibilidades y se debe además establecer otra política penitenciaria

estaba dirigida por criterios de venganza nuestra pregunta es cómo pretende enfrentar la asunción y gestión de

líneas generales de política de ejecución penitenciaria aproximación a un modelo para la cav y en el se puede leer

en materia de ejecución de la legislación penal y penitenciaria del estado este informe habla además de establecer un calendario de establecer un plan director de consensuar en cierta manera con los grupos parlamentarios también cómo se puede hacer esta transición

comisión desde aquí lo que le quiero preguntar es cómo la va hacer operativa

euskadi cuenta con el que probablemente sea el mejor modelo de protección social en españa

medios más altos de españa y a la cabeza de ellos está gipuzkoa sin embargo en gipuzkoa hay unas veinte mil personas que no pueden hacer frente a la factura de la luz y el gas

así que por mucho que nuestro sistema sea mejor que otro por mucho que los salarios medios sean más elevados que nuestro entorno

hace una semana en el pleno aprobamos atender a esta realidad acordamos reclamar al gobierno de españa una regulación eléctrica que no empobrezca más a los hogares pero acordamos también que tanto el ejecutivo de españa no resuelva esta cuestión

haga todo lo que está a su alcance para impedir que a nadie le corten el suministro energético por razones económicas sobrevenidas porque no podemos conformarnos con los mejores indicadores económicos

cómo va afrontar el cumplimiento de este mandato parlamentario eskerrik asko rojo andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

antes de que el mandato parlamentario aprobado el jueves veintisiete de febrero cuatro días antes llegará al gobierno vasco y pide respuestas al gobierno

de que hayamos recibido las preguntas y lo que haya sido la resolución del pleno del parlamento vasco pide respuestas por lo tanto al gobierno que no sabe ni a quién afecta la situación planteada

y podría parecer por lo tanto que hay o que cabría pensar en una evidente

no lo voy a hacer porque sino tendría que decir que así no se construye un servicio público de compromiso

efectivamente podríamos hablar de los indicadores en comparación con otras comunidades autónomas y podría hablar por lo tanto que aquí atendemos a las personas más necesitadas con hechos y no lo diría yo solamente sino que lo dice el informe funcas dos mil catorce

donde dice que euskadi tiene los menores niveles de desigualdad y el índice de pobreza más bajo de todo el estado en cualquier caso

y en las que cabe la resolución aprobada por el pleno del parlamento vasco ya hace quince días el pasado año dos mil trece

ha destinado cuatrocientos treinta y cinco millónes de euros a la renta de garantía de ingresos y a las ayudas de emergencia social

invertimos cuatro veces más en términos absolutos que la siguiente comunidad autónoma y le recuerdo y esto es lo importante en cuanto a las medidas en relación a la pregunta que usted formula le recuerdo que estas ayudas incluyen por ley

incluyen por ley los gastos de energía y le cito el artículo cuarenta y cuatro punto dos de la ley aquí hemos dado respuesta a los problemas de desahucio aquí en plena crisis hemos incrementado en un dieciocho coma cinco por ciento

hemos pasado de diecisiete coma tres millónes de euros en el año dos mil doce a diecinueve millónes en dos mil trece seis veces más que la siguiente comunidad autónoma

pero insisto y le quiero recordar que las ayudas que están contempladas en los programas del propio gobierno vasco incluyen por ley los gastos de energía

sí gracias presidenta lehendakari usted estuvo en ese debate y votó en contra

y de lo que aquí se pedía y yo también o este partido político podría decir que a usted no le preocupa la pobreza energética pero tampoco lo voy a decir

porque las hay y son familias que no están dentro de la renta de garantía de ingresos estamos dispuestos a ayudar a esas familias o no es la pregunta a la que hemos venido a decir

y el gobierno viene con su libro y da igual lo que aquí se pregunte ustedes dicen no voy a hablar de las medidas que vamos a poner en funcionamiento

es que la pregunta de este grupo parlamentario es qué medidas va a poner su gobierno a partir de un debate parlamentario concreto

porque los socialistas estamos dispuestos a colaborar activamente en cualquier tipo de solución porque creemos que estas familias no deben esperar porque no pueden esperar

aprovechando las múltiples vías de contacto con el gobierno de españa para forzar una decisión las respuestas fueron las alegaciones presentadas a la reforma

ustedes están muy preocupados por las empresas vascas y deben hacerlos es su responsabilidad pero qué pasa con los ciudadanos

es a esas familias a las que se refiere la pobreza energética porques esas familias no reciben la ayuda para pagar las facturas y es a esas familias a las que se les corta la luz y el gas

a mi grupo le sorprendió el voto negativo del partido nacionalista vasco es el mismo partido que en madrid unió su voto con el resto de la oposición para pedir al gobierno de españa que actuara en este tema

y conocemos como cruz roja y cáritas están ayudando a afrontar las facturas de muchas familias por un problema que además es de los llamados silenciosos porque afecta a colectivos que no se quieren reconocer en la pobreza por nuestra parte seguiremos insistiendo porque con nuestra insistencia fuimos capaces de encontrar una vía para que nadie se quede sin medicinas

o su hogar por no poder pagarlos la realidad es que los salarios han bajado y los costes de energía han subido

según un informe que publica el departamento de hacienda sobre desigualdad en la distribución de la renta el salario neto ha bajado casi un cinco por ciento debemos dar solución a los problemas

que le diga que esto no se hace por la insistencia del partido socialista como afirma usted en su pregunta

que lleva más de dos décadas funcionando en euskadi usted en su intervención parlamentaria hoy no ha querido compararse con otras comunidades autónomas

puso como ejemplo andalucía y dijo que presentará una propuesta concreta en junio que está elaborando un informe

mire el gobierno vasco ha adoptado medidas y las vamos a seguir adoptando hechos y no palabras señora rojo cuatro veces más que la siguiente comunidad autónoma tienen que encuadrarse esas medidas en el marco de protección social con que contamos es decir en los programas sociales en los programas vigentes y en el escenario presupuestario aprobado por esta cámara eskerrik asko

señor lehendakari egun on señores consejeros señorías como todo el mundo sabe en esta cámara y muy pocos saben fuera de esta cámara este parlamento aprobó la

pero en definitiva para analizar el autogobierno y profundizar en la idea de tener un nuevo estatus una reforma del estatuto

su constitución con los votos del partido nacionalista vasco y con el apoyo del partido socialista aquí tuvimos la oportunidad de escuchar los motivos y los argumentos políticos que defendieron los grupos parlamentarios el motivo de esta pregunta señor lehendakari es porque lo razonable es conocer también cuál es su opinión

representante el máximo dirigente político de esta comunidad autónoma es el lehendakari y además está sustentado por uno de los grupos políticos que han apoyado

pero lo que queremos es saber cuál es su opinión para qué cree usted que hay que reformar el estatuto de autonomía cuál es el objetivo político de la reforma de ese estatuto de autonomía

para que deba ser reformado porque usted en esta cámara no sí ha dicho cosas muy importantes sobre las que también nos gustaría conocer en esta cámara el contenido de esas afirmaciones porque usted ha dicho que en dos mil veinte euskadi tendrá un nuevo estatus político respetado por las instancias del estado

seis años sobre una reforma una hipotética reforma del estatuto que ya no es reforma del estatuto sino que es nuevo estatus político usted ha afirmado

porque hay que dar respuesta a un contencioso político no resuelto nos gustaría saber cuál es el contencioso político no resuelto y ha dicho también que quiere lograr que euskadi dentro de seis años sea consciente de su identidad señor lehendakari esto también merece una explicación porque entenderá que nos suene

euskadi es consciente de su identidad o en todo caso los vascos somos conscientes de nuestras múltiples identidades a nosotros nos gustaría saber cuál cree usted que es la identidad vasca

por ser conscientes gracias a su iniciativa y gracias a esa reforma del estatuto porque si tenemos que esperar a un estatuto para ser conscientes de nuestras identidades
poca consideración tenemos de los vascos y de la propia euskadi muchas gracias eskerrik asko sémper

legebiltzarburu andrea señora presidenta pensaba que la pregunta era qué valoración le merecería al lehendakari una propuesta de reforma estatutaria

y mire quiero hablar de la legalidad vigente y cita usted la constitución de mil novecientos setenta y ocho

y le digo que han pasado treinta y seis años y la realidad es distinta señor sémper

calló el muro de berlín se han creado nuevos estados en esta europa

un acuerdo para dar cauce democrático a una realidad nacional ha cambiado españa también señor sémper se ha demostrado que se pueden reformar los estatutos de autonomía

política para hacerlo y a cambiado también euskadi señor sémper está desapareciendo eta y la amenaza del terrorismo vivimos un nuevo tiempo político y yo creo que esta cámara es la mejor demostración de que también ha cambiado euskadi sin embargo es verdad que hay cosas que no han cambiado en treinta y seis años y apelando a lo que es la legalidad vigente señor sémper se sigue negando la realidad plurinacional del estado se sigue negando y el estatuto de gernika apelando a la legalidad vigente sigue incumplido señor sémper

noventa y tres este parlamento aprobó el informe de transferencias pendientes y lo hizo con el apoyo de su grupo señor sémper lo hizo con el apoyo de su grupo y desde entonces han pasado cuatro gobiernos dos de su partido

legalidad vigente sigue sin cumplirse habla usted de legalidad vigente pues ahí tiene la oportunidad de cumplirla

no la cumple el gobierno español no la cumple nosotros hemos hecho un planteamiento con todas las garantías políticas y democráticas lo hemos hecho en el parlamento propiciando la participación de todos los grupos creando una ponencia específica de autogobierno vivimos una nueva realidad y la legalidad ofrece alternativas políticas si compartimos la voluntad de propiciarlas señor sémper hablando de legalidad vigente

mecanismo de reforma y lo hace lógicamente dentro de la legalidad vigente

que vivimos una nueva realidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

siento haberle roto el guión de respuestas señor lehendakari no era mi intención creo que al final los debates pueden ser abiertos y que

parlamentarismo en buena medida es eso también no responder a guiones preestablecidos

nos la conocemos porque hemos debatido sobre ella en múltiples ocasiones y conocemos cuáles son las posturas de unos y de otros y de la dificultad que tenemos para coincidir incluso en análisis objetivos

pero cuál es su opinión de futuro por qué hay que reformar el estatuto de autonomía

de cuál quiero saber su opinión su criterio político porque lo tendrá usted es un líder político cuál es su opinión a dónde nos quiere llevar a los vascos

abierta al futuro en la que las identidades se respetan se entienden no como algo que nos separa y nos diferencia

sea aceptada porque es individual e imposible homogeneizar ese es el mundo efectivamente señor lehendakari al que vamos pero da la sensación oyéndole a usted que quieren homogeneizarnos que nos quieren abrir los ojos a los vascos

diciéndonos cuál es nuestra identidad cuál es su opinión señor lehendakari eskerrik asko

la he expresado aquí en otros plenos que hemos celebrado plenos que hemos celebrado no solamente de control al gobierno en lo que son las posturas también de programa de gobierno del gobierno vasco no me venga usted con que hablo fuera de esta cámara cuando lo he expresado el primero siendo candidato a lehendakari en esta cámara

un acuerdo que reconozca la realidad nacional de euskadi identidad única que usted pretende la realidad nacional de euskadi que nos permita actualizar y crecer en autogobierno que defina un sistema de garantías y la bilateralidad efectiva en las relaciones con el estado este es el meollo de la cuestión de la propuesta que plantea el grupo nacionalistas vascos y yo como lehendakari la defiendo y la presenté como candidato a lehendakari señor sémper en este mismo foro nuestra aspiración es alcanzar un nuevo acuerdo político

y que sea refrendado por la sociedad vasca y que sea respetado con todas las garantías señor semper y ese acuerdo creo que es posible y solo requiere una condición

asumir que nos corresponde a quienes hoy representamos la voluntad popular responder con altura de miras a la oportunidad histórica que adjuntamos responder a esta tarea pendiente

sí gracias presidenta buenos días señor lehendakari el viernes veintiuno hace dos semanas los verificadores de cartón de eta

llevaron a cabo su representación teatral su farsa su paripé pantomima eta y sus verificadores de cartón de común acuerdo montaron un video en el que dos etarras mostraban cuatro armas

en lo que pretendieron vendernos como una entrega de armas histórica por parte de eta después supimos que los etarras metieron las armas en una caja de cartón

antes usted mismo y algunos partidos políticos recibieron con honores a estos enredadores y legitimaron de este modo mediático y la pantomima de eta legitimaron

después del teatro usted acudió raudo y veloz a madrid

que fueron citadas ante la audiencia nacional es ciertamente curioso porque no se le recuerda gesto semejante para defender a las víctimas del terrorismo sin embargo acude a madrid para defender a los verificadores enredadores de eta evidentemente merece una explicación porque usted de ese modo al actuar de esa manera lo que hizo fue avalar

impulsado por eta y sabemos cual es el objetivo de eta mediático y con su negativa a disolverse y a entregar las armas sabemos cual es el objetivo presionar

para lograr más ventajas políticas e impunidad para sus presos y para presionar también al conjunto de la sociedad y a los partidos políticos y usted se suma a esa pantomima en nuestra opinión es un hecho extraordinariamente grave y por eso le preguntamos si considera que puede seguir siendo lehendakari

señor maneiro no sé si por edad no sé si por recorrido político no sé si por representación política

creo que he estado en muchos más actos en honor a las víctimas del terrorismo que los que usted haya podido estar y no le paso la mención a las víctimas del terrorismo

los vascos y vascas y asumo esa representación señor maneiro trabajo

con la comisión internacional de verificación desde hace años y hoy estamos mucho más cerca del desarme total del reconocimiento del daño injusto causado y la disolución definitiva de eta que de eso no hablaba

hace dos semanas hemos apoyado a los verificadores porque están trabajando en avanzar en estos objetivos señor maneiro y como lehendakari respondo

respondo también a la opinión mayoritaria de esta cámara señor maneiro

ante la audiencia nacional sesenta y cuatro de setenta y cinco parlamentarios señor maneiro sesenta y cuatro de setenta y cinco parlamentarios el ochenta y cinco por ciento de esta cámara ochenta y cinco por ciento

de actores principales y secundarios no sé qué papel se reserva usted para sí mismo señor maneiro pero no pretenderá ser ajeno a lo que dice criticar porque no hace más que promocionar cada semana este debate

el titular ruidoso el aplauso fácil de su coro mediático en españa usted

y propaga y lo hace en exclusivo en beneficio propio señor maneiro eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

gracias presidenta no se ponga usted nervioso señor lehendakari y asuma el ridículo que hizo usted hace dos semanas al avalar mediático impulsado por eta y esa falsa entrega de armas que no fue tal se metieron las armas en una caja de cartón

al de acudir a madrid para defender a unos verificadores no se le recuerda a usted para defender a las víctimas del terrorismo no se le recuerda no ha tenido un gesto semejante nunca de verdad señor lehendakari visto lo visto y quince días después de verdad

no va a pedir disculpas no va a reconocer el error no va a reconocer aquí ante todos que aquello fue

que presionar al gobierno de españa para lograr ventajas políticas cuándo va a exigir a eta su desaparición definitiva e incondicional para siempre

volver a plantear diálogos con eta qué le parecen a usted las declaraciones de jonan fernández que acusó al gobierno de someter a la sociedad vasca a un estado de convulsión permanente simplemente por exigir

se disuelva y entregue las armas qué le parece a usted estas declaraciones

definitiva e incondicional y decir claramente que si quiere entregar las armas puede hacerlo porque es una falacia esto que algunos pretenden vender de que eta quiere entregar las armas pero no puede es una falacia y usted tiene que decir también aquí que eso es una falacia

es porque no quiere reconozca lehendakari el error cometido eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro con toda la tranquilidad del mundo y en relación nuevamente a las víctimas del terrorismo

hayamos tenido de acompañamiento a las víctimas del terrorismo que algunas me han tocado de cerca señor maneiro más allá de eso le puedo recordar mi presencia en el congreso de los diputados en el año noventa y ocho

cuando se aprobó la ley de víctimas del terrorismo para el estado español por unanimidad y el trabajo que el partido nacionalista vasco hizo para la aprobación de esa ley de víctimas del terrorismo del estado como ejemplo y no voy a avalar nunca la utilización irresponsable de un tema tan serio como es el de la paz

la labor de la comisión internacional de verificación a la que considero fiable y segura para conseguir el fin que perseguimos desde hace años señor maneiro

fundamental para esta sociedad y su futuro de paz y convivencia trabajo por un desarme y una disolución de eta señor maneiro con garantías afronto este problema desde la responsabilidad y no desde la frivolidad hemos apoyado al grupo de verificadores el ochenta y cinco por ciento de esta cámara

los quiera caricaturizar y con una trayectoria de responsabilidad contrastada su gestión es fiable y es seria nunca

habían afrontado una situación como la vivida ante la audiencia nacional y en cualquier caso señor maneiro su compromiso el de la comisión internacional de verificación

y espero que sea una garantía para avanzar en el objetivo deseado del desarme total y la disolución completa e incondicionada de eta señor maneiro eskerrik asko

kanpo utzi el lehendakari ha dicho que está convencido de que la

el arraigo como el compromiso social del banco pero cómo cómo se va a garantizar

de kutxabank en qué se basa esa absoluta confianza que manifiesta el lehendakari a un banco cuyas participaciones mayoritarias no son

para incidir en las decisiones apelar a la buena voluntad de los capitales kontrol ekonomikoa galduta nola bermatzen da kontrola

referencial y este tipo de decisiones ha tenido una consecuencia más no solo la pérdida de control político sobre una empresa sino ha tenido

y me quiero referir a ese tema ahora precisamente en presencia de los trabajadores de euskaltel porque es rentable

y unos beneficios netos de ochenta y cuatro coma uno millónes

los beneficios netos superaron en un cincuenta y cuatro por ciento al coste laboral que eso es terrible

que el propio coste laboral y las ganancias de este último año en el año dos mil trece han sido de cincuenta millónes de euros y a pesar de ello afronta un conflicto laboral

y que afecta no solo a los trabajadores propios de euskaltel que reclama que no hay esta realización sino que afecta también a las subcontratas como aplica que también ha salido a protestar se han manifestado para que se respete sus derechos laborales

a pesar de tener beneficios millónarios crear país atender un servicio de comunicaciones estratégico no

que es el objetivo que tiene cualquier empresa privada que no tiene una voluntad de servicio público ganar dinero horregatik

gauza txarrak esango nituzke decíamos el gobierno como siempre ha trabajado y trabaja por poner en marcha

de que el sector telecomunicaciones era importante para euskadi y había que impulsarlo y ahí toma el gobierno vasco una participación importante para poner en marcha esa empresa es cierto

una vez que la empresa consolida su trayectoria lo lógico es que el gobierno retire sus recursos y los lleve a otras empresas y a otras necesidades baina baita ere

en relación a la venta de euskaltel por parte del gobierno vasco se hizo en el año dos mil doce respetando

aprobada por la comisión de economía y hacienda del parlamento vasco en agosto del dos mil doce refrendada por este parlamento

vamos a hablar de cosas reales y que funcionan de todas maneras sobre esta red que como dice usted se valoraba en sesenta y ocho millónes de euros euskaltel ha realizado inversiones por valor

con el objetivo de llegar al máximo de ciudadanos al máximo de personas y al máximo de empresas

además más datos demuestran que el capital de la compañía sigue estando en su mayoría en euskadi el cincuenta y dos por ciento la mayoría absoluta del capital

lo que efectivamente demuestran los datos es que euskaltel es una empresa líder en el sector que hace inversiones

que actúa de tractora sobre otras empresas que es fuerte solvente con capital asentado en euskadi este hecho

que desde luego como gobierno en este momento no tenemos la más mínima intención de tomar participación en este capital puesto que ya la empresa es viable por sí pero me quiero remitir a unos datos que la propia kutxabank facilita por si puede servir para aclarar cosas en cuanto al arraigo de la empresa

en el momento en el que se quedan la participación tal como existe en este momento kutxabank en el cuarenta y nueve coma nueve iberdrola en el dos y el resto en otros fondos en virtud del cual

para la adopción de las decisiones estratégicas relevantes cualquiera de ellas se necesitará el voto a favor de kutxabank

aunque mantenga un uno por ciento luego a través de esa participación y a través de esa cláusula

evidentemente el arraigo queda en euskadi sin duda es parte del acuerdo de accionistas que nos ha transmitido la propia kutxabank que tampoco puedo contar mucho más porque se trata de un acuerdo privado pero eso literalmente figura en este momento euskaltel se encuentra compitiendo con operadores mundiales líderes mundiales y euskaltel es una empresa lider en el sector en euskadi es líder en internet de banda ancha o ultra rápida en televisión digital en telefonía fija

y es el operador que más crece en el segmento en el sector por tanto sigue siendo líder tractora e importante

atiende a más de cuatrocientos mil clientes vascos a los que presta diariamente más

uno coma tres millónes de servicios diariamente una compañía que crece año a año que va incorporando servicios que va incorporando tecnología y que está en la punta de lanza de todo lo que se supone tecnología en telecomunicaciones además gracias al compromiso de euskaltel con euskadi

autonomías uno de los lugares donde más concentración

y en un entorno de cambios tecnológicos que van además a una gran velocidad euskaltel necesita reforzar su competitividad tecnológica y su velocidad de adaptación al mercado para ello suscribe alianzas tecnológicas con empresa proveedoras

y que permiten cumplir el objetivo de encontrarse en la punta de esa lanza una decisión estratégica que no solo busca mantener el empleo en la propia empresa sino que busca que en euskadi se siga generando empleo en el sector de las telecomunicaciones que para eso se constituyó para que esa empresa fuera tractora de otras empresas del ámbito de las telecomunicaciones

sino como algo que tracciona del resto del sector evidentemente la gestión de la empresa con los trabajadores compete a la empresa es evidente pero en este momento considerar que el proceso de alianzas tecnológicas de trabajar porque el sector de todas las telecomunicaciones en euskadi avance y sea cada vez más competitivo sea un peligro o un riesgo para el país desde luego me parece no saber dónde estamos trabajando ni a qué nos estamos enfrentando

las alianzas se suscriben con empresas de referencia que nos permiten ubicarnos en el mundo

pero que estén abiertas al mundo y para ello hay que tomar una serie de decisiones estratégicas arraigo sí porque está garantizado pero apertura al mundo y en este contexto

y el resultado será que seguirá siendo una empresa tractora en el sector de las telecomunicaciones desarrollando su actividad en muchos más ámbitos en los que actualmente lo hace

que continúe en la estrategia de arraigada en euskadi mantener empleo y hacer que crezca no solo dentro de la empresa sino en el resto de empresas del entorno creemos sinceramente que
el arraiga como usted preguntaba está garantizado en este momento eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

acuerdo de accionistas mientras kutxabank sea titular de acciones de euskaltel para la adopción de las decisiones estratégicas relevantes se necesitará el voto a favor de kutxabank cualquiera que sea su participación

sobre temas de personal evidentemente nosotros no tomamos parte no somos parte de euskaltel y habla de subcontratar y de generar problemas y lo que estamos hablando es que euskaltel es una empresa que tracciona de todo

que no solo euskaltel tiene que crecer que tiene que crecer todo el sector de telecomunicaciones en euskadi en este momento si algo va a ser importante a futuro va a ser el sector telecomunicaciones audiovisual electrónica todo eso para la generación de valor en todas nuestras empresas por tanto euskaltel crecer sí

a todo un sector muy importante y ese es su papel principal no solo ellos tienen que crecer tenemos que conseguir alimentar todo el sector para que realmente euskadi esté en primera posición y en eso está trabajando euskaltel y en eso va a tener toda la ayuda del gobierno vasco toda porque consideramos que es estratégico para este país no solamente tener esa banda ancha que tenemos y llegar al ochenta y cinco por ciento de la población es llegar al cien por ciento

y que nuestras empresas utilicen esa red esas posibilidades todos los servicios que van sobre esa red para situarse en punta tecnológica eso es lo que tenemos que hacer

de reforma de la administración en local creemos que tenemos un gran reto por delante en este momento también aquí en euskadi un reto

y ese reto es evitar sortear y eludir los aspectos más regresivos de esa ley y apostar por un municipalismo de convicciones

sea el eje central y no solo un argumento retórico y estas no son nuestras palabras no son las palabras de eh bildu evitar sortear y eludir los aspectos más regresivos de esta ley

eudel lo está pidiendo eudel también por eso queremos hacer esta interpelación al gobierno vasco para saber cuando se traiga

de los servicios públicos se van a evitar sortear y eludir besterik ez eskerrik asko

el texto refundido inmediatamente posterior toda la legislación de desarrollo dictada con carácter básico por gobiernos socialistas

eran ya potencialmente vulneradores de la autonomía local hasta límites increíbles

muchos tomos muchos tomos por parte de quienes ahora defienden la autonomía local

no arranca de esta ley esta ley se inserta en un marco normativo básico que había sido dictado durante los

el parlamento vasco insta al gobierno vasco a realizar las gestiones necesarias para que cualquier modificación de la legislación básica en materia municipal refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco eta honetan

la puebla del arganzón no beste joko batean zegoen guk

ante los profesores también de derecho incluso ante los más pedantes

y saber qué dicen los textos y tener claro que el coste efectivo es verdad es coste efectivo no es coste estándar se va a aplicar aquí también y la pregunta que quería hacerles si ustedes lo van a aplicar tal y como viene

oso lan txukuna egin dutela yo leo el artículo treinta y cuatro que recoge

hay más artículos pero es el que más ampliamente recoge los acuerdos con el partido nacionalista vasco

y empieza de acuerdo con la disposición adicional primera de la constitución es decir está recogiendo algo ya aprobado en el año setenta y ocho tiene mérito

negociar algo que se recoja algo que está aprobado en el año setenta y ocho punto dos

hace unos cuantos años también se aprobó esto negociar que se recoja algo que ya está recogido

en el ejercicio de las competencias que el estatuto una vez más se repite continuamente reconocer

existía pero vamos al del coste estándar y qué es lo que dice a dichos efectos las diputaciones forales

desarrollarán no establecerá ni fijarán los criterios

desarrollarán las diputaciones van a ser las recaderas de lo que diga el ministerio de hacienda estatal

porque desarrollarán y el artículo ciento dieciséis dice clarísimamente que será el ministerio de hacienda quien establezca esos criterios por lo tanto la pregunta es la ley municipal

de esta manera y en cuanto a las competencias

en este caso de que se fijen aquí las competencias pero por ahí va la pregunta también la ley municipal va a reconocer

lo que dice la ley estatal que suprime directamente y deja en manos de las diputaciones algunas competencias porque para algunos ayuntamientos y para la autonomía local es lo mismo que sea madrid quien le quite competencias o que sean las diputaciones eso es un ataque a la autonomía local

fíjese ahora que los portavoces del partido socialista han dado por supuesto que su iniciativa aquí para promover un recurso en defensa de la autonomía municipal incorporan ayuntamientos gobernados por eh bildu por cierto no sé si usted ha leído la ley orgánica del tribunal constitucional pero dice que cuando se plantea un recurso en defensa de la autonomía local hace falta que se incorporen la séptima parte de los ayuntamientos que supongan la sexta parte de los ciudadanos pero no en ayuntamientos europeos españoles

banderas españolas en todas las balconadas de los ayuntamientos que gobiernan además caractericen a sus ayuntamientos y a su población como españoles

cerramos el círculo a quien le empieza a gustar ir a madrid es a eh bildu

el caso que menos le convenía precisamente a eh bildu el caso de la ley del aborto dice qué vamos a hacer en la ley del aborto lo que me gustaría saber es si sabino cuadra y rafa larreina van a votar lo mismo esto es lo que se pregunta en este país todo el mundo

me dice el coste efectivo el coste efectivo que ya no es el coste estándar lo van a definir en gipuzkoa la diputación foral de gipuzkoa

la diputación de gipuzkoa es la competencia para ese tema por tanto donde hay que plantear es en primer lugar en las juntas generales y usted me dirá usted va a proponer alguna iniciativa para que la

más o menos equilibrada en los tres territorios que va a ser diferente a que exige por orden ministerial el ministerio de hacienda para los municipios del estado sí lo voy a hacer

diputaciones a este respecto si la diputación de gipuzkoa por ejemplo me dice que será ella la que fije esto para los ayuntamientos guipuzcoanos pues tiene habilitación expresa por parte de la ley

pueden entrar jurídicamente en ese terreno no le impondré criterios en esta materia pero la responsabilidad es de la diputación de gipuzkoa en lo que a gipuzkoa se refiere después

la ley se está trabajando ya como consecuencia de la aprobación de la ley de racionalización el acuerdo entre las instituciones que también exigía esta cámara para presentar la ley municipal es absolutamente imprescindible y ese

este mismo mes voy a convocar he hablado ya con los representantes de las tres diputaciones y con los máximos responsables de eudel para convocar el consejo municipal de euskadi de manera que pongamos en común en el foro adecuado todos los retos que la ley de racionalización nos plantea a las instituciones competentes aquí en euskadi y podamos afrontar de la ordenación que tiene que acometer la ley municipal de manera lo más

por parte de las instituciones implicadas estas regulaciones que tenemos que afrontar aquí para los municipios vascos en un contexto completamente distinto al de los municipios españoles

de que los municipios de eh bildu se sumen como municipios españoles a los del partido socialista en promover un recurso de inconstitucionalidad por tanto voy a convocar para este mismo mes un consejo municipal de euskadi para que

de todas las instituciones que tienen algo que decir en esta materia por parte de eudel por parte de las tres diputaciones y por parte del gobierno

de cara a la definición a la clarificación del panorama competencial de los municipios que es imprescindible que lo hará la ley municipal cuando se apruebe definitivamente

la misma semana la próxima semana remitiremos a todos los ayuntamientos una instrucción

en relación con el marco competencial en el que a juicio del gobierno tienen que operar los municipios vascos que es distinto al de los españoles hasta en tanto la ley municipal no concluya la definición del marco competencial que finalmente les corresponde por tanto estamos trabajando estamos siguiendo los mandatos de esta cámara

con los pies en el suelo y resolviendo las cosas de manera que el impacto negativo de la ley de racionalización en los municipios vascos y su autonomía municipal sea el menor posible si hubiéramos hecho lo mismo que aralar hoy los municipios vascos estarían exactamente igual que los españoles muy mal

lehendakari como estaba previsto usted acudió el lunes de esta semana

españa dos mil catorce una cumbre que ha dejado al descubierto graves carencias políticas para dar seguridad a la ciudadanía y a los bienes como

producidos con enorme facilidad operativa y que merecen nuestro máximo rechazo nuestra máxima solidaridad

así como nuestro compromiso de exigir aclaraciones y responsabilidades pero esto ya está en marcha con otras iniciativas de mi grupo y lo abordaremos en otro momento una cumbre en la que el ministro de economía y competitividad luis de guindos había puesto muchas expectativas

señaló que en ella esperaba analizar la situación económica y la salida de la crisis para la que por supuesto según él encontrarían soluciones

explicaciones complementarias ya que lo publicado en los medios de comunicación se aleja y de qué manera de cualquier solución y más bien crea cierta alarma por la cantidad de testimonios

dejaron quienes intervinieron en ella y quienes opinaron en los medios alarma social porque las conclusiones que desde fuera hemos podido apreciar

de la contratación y debe profundizar en la reforma laboral así lo dijo la presidenta del fondo monetario internacional cuando afirmó que se necesitaban más reformas y volvió a señalar para ellas a los costes salariales así lo dijo el presidente del eurogrupo cuando le pidió al gobierno de rajoy tener valentía política para convencer a sus electores

más ajustes así lo dijo el secretario general de la organización para la cooperación y el desarrollo cuando afirmó que hay que insistir en la flexibilidad del mercado laboral

cuando señaló que era imprescindible mantener el rumbo de las reformas y así lo remató

que no abandonaría el amplio programa de reformas con estas aseveraciones a nadie bien intencionado se le escapa que sigue sin existir una apuesta política de salida de la crisis en términos sociales y sí una política para insistir en las recetas de ajustes y recortes que han producido

y sufrimos señor lehendakari fíjese hasta qué punto este foro solo era capaz de expresarse en términos de política conservadora y por ello injusta

déjeme que haga este paréntesis para señalar que tampoco hace falta exagerar que a cada cual lo suyo que usted empezó esta legislatura recortando por todos los lados y asumiendo un repliegue del sector público rechazando una reforma fiscal que le diera más recursos y reduciendo la inversión

sociales de manera más que notable y que esto le llevó a tener que retirar el presupuesto

una política de recortes copagos y repagos no ponía sumar los votos que necesitaba para aprobar ese presupuesto

varias políticas estratégicas que los socialistas defendimos y practicamos en el gobierno anterior y también en la actual legislatura por cierto políticas que no han servido entre otras cosas

que expresó en el foro y que mereció la calificación de social lehendakari si además de pactar estas políticas que ha hecho con nosotros

a discursos como el señalado con sus correspondientes matices sociales los socialistas estamos satisfechos de haberle ayudado a este cambio político y personal

como algunos señalaban y usted habrá podido leer en los medios ojalá que esto sea algo más que una necesidad para gobernar o un guión para competir electoralmente porque como usted sabe y ha quedado demostrado una vez más

mientras los que especulan se vuelven a sus casas plácidamente los que están sufriendo la crisis la sufren igual o más y tienen además

por su futuro señorías para quienes consideran que los especuladores son legítimos propietarios de sus recursos la crisis económica es la consecuencia de haber gastado mal o de haber gastado más de lo que se debía

existentes están bien distribuidos que los que tienen mucho se lo merecen y que los que tienen poco también se lo merecen es fácil echar la culpa al déficit al desempleo es fácil echar la culpa del déficit

a los recortes y a los repagos a la poca productividad a los altos

a una fiscalidad excesiva o a un gasto público exagerado para quienes el sistema bancario es dios que la prima de riesgo haya estado en seiscientos cuarenta y nueve puntos básicos resulta razonable ya que por derecho divino quienes controlan

un mundo injusto mal repartido mal gestionado movilizarse alzar la voz y presionar para influir en impedir

resulta una necesidad como así lo hemos expresado en las movilizaciones pacíficas y en los pronunciamientos de estos días lehendakari resulta insultante que

tan poseído de la verdad reproduciendo recetas que la sociedad en su mayoría rechaza porque han fracasado

el mayor daño económico y social de sus vidas innumerables ciudadanos resulta insultante esta cumbre sin autocrítica sin autocrítica por no haber querido parar el

sin autocrítica por la política bancaria de estrangulamiento a varios países sin autocrítica por las consecuencias de sus

que nos llevaron de la fortaleza bancaria al rescate encubierto que estamos pagando a escote entre todos sin autocrítica de esa cumbre por la política de la austeridad

a tanta destrucción de empleo y de tejido empresarial por la ausencia de crédito y por los insoportables precios

no se sientan máximos responsables del mal uso de ese dinero antes y ahora la situación económica y social es de máxima gravedad en nuestra sociedad

hay una afectación tremenda sobre algunos valores fundamentales para la convivencia las mentiras que se han contado sobre cómo se ha gestado esta crisis la falta de escrúpulos de los especuladores la cultura de la resignación con la que se ha querido impregnar a la ciudadanía

aunque no haya resultados que la avalen son claros ejemplos de una cultura brutalmente antisocial y de una falta de valores para la convivencia colectiva lehendakari existe alternativa claro que existe alternativa pero para eso primero tenemos que sacudirnos

a la que se ha sometido a la mayor parte de la ciudadanía por excesos que cometieron algunos pocos que no quisieron controlar y remediar algunos pocos más y que sin embargo han sido transferidos

de que nuestro modelo de desarrollo es posible con otro reparto de la economía con otra redistribución de la riqueza con otras políticas diferentes a las conservadoras

pero que muy pronto se van a renovar y si la ciudadanía quiere

estamos desde el inicio de este año bajo la presión de la propaganda de la recuperación criticar la recuperación en los términos en los que se expresa con los datos que se dan y con las políticas que se hacen es no ser patriota desear lo peor para el país y además no enterarse de que todo está cambiando

es hablar y hablar de la recuperación lehendakari usted ha estado en ese foro ha estado rodeado de los que creen que saben más de economía

a la crisis ilústrenos cuéntenos qué avances concretos qué medidas concretas

para crear empleo para acceder al crédito doméstico y empresarial para luchar contra el fraude fiscal para limitar la acción de los paraísos fiscales para que exista una fiscalidad común

para flexibilizar el déficit y para mejorar la atención pública a la ciudadanía que lo necesita lehendakari comprenda que tengamos necesidad de saber sobre la flexibilización del déficit porque como usted sabe mientras el gobierno de patxi lópez se endeudó en dos mil doce en novecientos setenta millónes

y para el año en curso tiene autorizados mil trescientos quince si le parece dejamos para otro momento

lo que recaudaron pero sí es este el momento de saber si el foro global ha tomado en cuenta o no la flexibilización del déficit porque de él pueden depender muchas políticas públicas

global españa dos mil catorce cabe algún tipo de política desde euskadi que pueda contribuir a una recuperación social de la crisis cuéntenos si hay alguna expectativa de verdad o si hay más de lo mismo cuéntenos si ha visto y si las ha visto cuáles son las soluciones que el señor de

legebiltzarburu andrea señor prieto le dejo

siga usted pretendiendo construir un relato sobre lo que haya podido ser las pretensiones de este gobierno o

no quiero entrar en lo que han podido ser los recortes los repliegues el rechazo de la política social porque tendría que recurrir también a lo que fue el mandato anterior que usted gobernaba con el gobierno vasco apoyado por el partido popular me habla usted también de la flexibilización del déficit de un objetivo del déficit propuesto por el partido socialista obrero español y votado junto con el partido popular en la reforma exprés de la constitución

de relatos que el partido socialista de euskadi pueda necesitar señor prieto en todo caso la semana pasada debatimos y aprobamos en esta cámara una proposición no de ley

del que usted hablaba y recuerdo su intervención propugnando una participación del gobierno vasco con un perfil propio y creo sinceramente haber respondido con una intervención en dicho foro consciente del foro en el que me hallaba y no compartiendo la mayoría de las cuestiones que allí se dijeron señor prieto

por una incidencia del partido socialista de euskadi sobre mí

por otro lado señor prieto hace exactamente un mes el pasado siete de febrero fui interpelado también

y una vez finalizado el foro el lunes pasado me reafirmo en la conveniencia de haber tomado parte respondiendo a las intenciones

esta es la actitud con la que hemos afrontado este foro lo que yo personalmente he querido representar con mi participación en este foro económico celebrado en bilbao primero

asistentes a dicho foro segundo con el ánimo de escuchar y convendrá conmigo en lo relativo a

no quizás de las personas que figuraron en las exposiciones de la mañana sino más bien

somos un país pequeño y necesitamos aliados para nuestros proyectos internacionales y el tercero o la tercera de las razones de la participación en dicho foro era también con un objetivo era dar a conocer nuestro propio modelo de desarrollo un modelo

solamente el partido nacionalista vasco es algo que hemos construido conjuntamente entre ustedes fundamentalmente partido socialista de euskadi y partido nacionalista vasco

representados en dicho foro en dicha cumbre celebrada el lunes pasado avancé en esta cámara

asentado en el crecimiento sostenible y el desarrollo humano y me preguntaba usted en su interpelación por las conclusiones emanadas del foro bueno quiero recordarle señor prieto

de lo que pudieran ser las conclusiones del encuentro sí le puedo confirmar que a día de hoy todavía no las hemos recibido si es que las hay y sí me comprometo en todo caso hacérselas llegar a su grupo y al resto de grupos

podría hablarles sí podría hablarles señor prieto de lo que me parecieron cuestiones destacables de las intervenciones de la señora lagarde del señor barnier del señor almunia del señor

del señor de guindos podría hablarle de estas cuestiones pero no creo que son

cumbre le voy hablar por lo tanto no de las conclusiones del foro sino de las que yo mismo he obtenido las mías personales

y comienzo por contrastar que hemos cumplido un objetivo importante las personas asistentes han podido conocer mejor la realidad económica diferenciada en nuestro país una euskadi que ha apostado siempre por la industria y la empresa

sus políticas publicas en apoyo a la economía productiva y que apuesta por la ciencia la tecnología y la innovación como motor económico de futuro ha podido conocer quien haya participado en dicha cumbre algo mejor la realidad institucional y financiera propia de nuestro país han podido conocer también el origen histórico del concierto económico que se

han sabido por lo tanto que se trata de un instrumento jurídico financiero genuino y hemos podido recordar que este concierto económico vasco también forma parte de europa todo esto

las personas asistentes también han tenido la constatación de que en euskadi contamos con una economía abierta

escuchar también a empresas vascas o representantes también de organismos internacionales que han reconocido la agrupación la presencia y la ambición internacional

y también han sabido que vivimos un momento histórico trascendental también me parece importante ligarlo a lo que pueda ser el desarrollo económico el desarrollo humano el crecimiento sostenible

y sobre este marco general hemos podido dar a conocer cómo estructuramos en euskadi el modelo vasco de desarrollo económico insisto durante muchos años trabajado conjuntamente entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi un modelo de compromiso social del que hemos destacado el desarrollo humano el crecimiento sostenible al servicio del empleo

han sabido quienes asistieron a la cumbre el lunes pasado que no se trata de palabras sino que estas prioridades forman parte de nuestra política económica lo han conocido y puedo confirmarle

no puedo hablar por lo tanto de las conclusiones del foro pero sí le puedo adelantar que en el mismo se ha planteado

así como a la apertura a los mercados exteriores de las empresas vascas

que ha sido constatada esta misma semana por un informe de la comisión sobre la evolución

en la que se reconoce el papel tractor de euskadi y por otra parte se ha puesto de manifiesto la capacidad de transformación urbana y modernización de bilbao y el conjunto de nuestra comunidad el propio presidente del eurogrupo afirmó textualmente en su intervención que la economía vasca está actuando muy bien

del eurogrupo y la citó como referencia además de destacar también el proceso de revitalización de bilbao como un ejemplo en europa

no puedo responder por las conclusiones del foro pero sí comparto determinadas preocupaciones que se han planteado por los participantes en el mismo le citaré cuatro cuestiones

la pregunta que usted me hacía al final de su intervención sobre si hay algunas cuestiones que me han podido parecer interesantes bueno me ha parecido interesante

a las pequeñas y medianas empresas tomando como referencia el modelo alemán

la necesaria apertura al exterior e internacionalización de la economía y la empresa

de las intervenciones que he podido leer y que he podido escuchar son cuestiones que forman parte además de la política económica del propio gobierno vasco y es que mi intervención

una acción política orientada por el compromiso social algo que no escuché de las intervenciones que allí se

en la representación institucional que allí tenía lugar el modelo vasco de crecimiento sostenible y desarrollo humano es hoy un poco más conocido por esas personas que no tuvieron esta cuestión como preocupación creo por último señor prieto haber cumplido fielmente el espíritu de la resolución de esta cámara y por último

con el que usted ha empezado su intervención desgraciadamente el lunes durante la celebración del foro en bilbao y escudándose en una movilización de protesta legítima un violento grupo de encapuchados ha puesto en práctica el más radical de los vandalismos la imagen de bilbao ha quedado empañada por la actuación de un reducido grupo de vándalos

se han vivido situaciones de angustia entre trabajadores del comercio y los servicios porque se han atacado todo tipo de establecimientos mobiliario y transporte urbano así como también edificios públicos estos hechos y lo reconozco han empañado la contestación pacífica del foro o al foro

el día anterior como el mismo lunes y no cabe duda de que ha empañado también la imagen internacional de la ciudad

y vuelve a condenar estos hechos y ha tomado todas las medidas para que las personas responsables de este vandalismo ciego sean conducidas ante la justicia y por lo que pueda ser

ha solicitado la comparecencia ante la comisión correspondiente en este parlamento espero que

como hoy también estará teniendo lugar ya la reunión en estos momentos en bilbao entre las asociaciones de comerciantes el ayuntamiento de bilbao y el departamento de seguridad

presidenta lehendakari no se moleste porque

con nuestros acuerdos con nuestros compromisos usted puede también mejorar y puede mejorar su perfil social en relación a lo que fueron sus primeras intenciones de legislatura y lo que finalmente se está practicando al fin y al cabo usted es

máximo de esta sociedad y por lo tanto a este parlamento debe venir con una actitud propia porque para eso pertenece a un partido político pero también con una actitud abierta

para ser el máximo representante de todos los ciudadanos y ciudadanas vascas por lo tanto en fin tómelo con toda la naturalidad

todos vamos cambiando y mejorando o intentamos por lo menos en la medida en que asumimos políticas

un conjunto de políticas que nosotros veníamos haciendo y defendiendo desde hace mucho tiempo

a este país unas posibilidades que cuando usted empezó la legislatura no tenía y que en estos momentos las tiene y bueno señalar esto yo creo que es algo que lo puedo hacer yo

que este es un discurso mío más o menos con el que me recreo como ha venido a plantear aquí en fin ya sabe usted aquello

tiene una trayectoria pues muy sabia en los últimos meses desde que empezó esta legislatura y más en concreto a los cuatro meses de esa legislatura

la han considerado como una intervención socialdemócrata otros esquizofrénica por una serie de circunstancias que se han ido produciendo pero bueno esto es ya para opinan desde otros lugares lo que yo le planteo es qué expectativas qué perspectivas ha visto usted ahí porque claro usted ha sido

sino que ha sido nuestro representante en ese foro nuestro representante

amplio de los sentidos como lehendakari en esta cámara donde le estamos pidiendo un poco la valoración de lo que se ha planteado en este foro porque fíjese

que allí se hablara de que el banco central europeo pudiese ayudar

y hoy se dice en la prensa que el banco central europeo ha renunciado a hacer por lo menos de momento esa política hoy mismo

ya están pasando otras cosas o por ejemplo en esta semana como usted sabe un grupo de economistas independientes alemanes

no son las que se están dibujando desde españa por cierto

de los economistas independientes alemanes lo apoya el fondo monetario internacional lo apoya el banco

es decir que lo comparten foros muy importantes con lo cual en este momento en el que estamos invadidos por la propaganda de la recuperación y con un foro que parecía que tenía que crear algún tipo de expectativas todas las noticias que se han producido posteriormente desde el punto de vista económico

son negativas para el empleo son negativas para el crecimiento son negativas para esa recuperación de la que se habla y claro que haya pasado una cumbre económica y que nosotros no tengamos una opinión que usted no tenga una opinión más hecha más rotunda pero no solo de lo que se ha planteado en ese foro incluso de lo que no se ha planteado

política reivindicativa de su gobierno cuál es la actitud política y reivindicativa de este país que ve que como parte de esa unión europea en una

en vez de salir ideas y soluciones lo único que salen son retrocesos que además esos retrocesos se agrandan con noticias que posteriormente son conocidas por ejemplo hoy hay dos datos más en la prensa kider se cierra y trescientos ochenta y ocho trabajadores van a la calle

un treinta por ciento menos que en el dos mil doce en fin estamos viendo datos

y mientras tanto como usted sabe si no hay una política europea que trabaje con el crédito que trabaje con planes de empleo que flexibilice el déficit

de otra manera mucho más tranquila la recuperación es imposible con las tasas de paro que hay en este país

hacer yo de lo que ha sido después del foro del lunes pues la verdad es que no sé en qué me tengo que centrar para darle respuesta a lo que ha sido su interpelación formulada de manera

ha empezado usted nuevamente en su segunda intervención con lo que que no se moleste usted con las aportaciones que desde el partido socialista le hemos hecho oiga señor prieto yo simplemente le he dicho que respeto

con los hechos que ha tenido el partido socialista de euskadi cuando ha gobernado en el mandato anterior con el apoyo del partido popular ni se corresponde con lo que el partido socialista obrero español ha hecho

ni se corresponde con las decisiones que conjuntamente con el partido popular ha adoptado para fijar un límite de déficit con una reforma express de la constitución construya usted el relato que usted quiera y no me

mis primeras intenciones no no mis primeras intenciones están aquí reflejadas en el debate de investidura y mis primeras intenciones están trasladadas

de este gobierno vasco que es muy anterior a lo que es el acuerdo entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

pero no me venga usted con lo que es las primeras intenciones cuando aquí hay una realidad que es un debate de investidura con unas intenciones manifestadas

corresponde y responde a lo que es ese planteamiento que de siempre ha tenido el partido nacionalista vasco y yo personalmente no me venga usted con que ahora nos hemos vuelto socialdemócratas no yo creo que tenemos

también bastante acuñado lo que es nuestro concepto de sociedad y nuestro concepto de compromiso social y nuestro concepto también de justicia social donde se enmarca

también socioeconómico del partido nacionalista vasco y si no tendría que decirle a usted también que mire si tan preocupado está por lo que es el planteamiento del partido nacionalista vasco recurra también a la ponencia económica del partido nacionalista vasco en el año mil novecientos setenta y siete ya en el año mil novecientos setenta y siete de aquello hemos aprendido algunos

me pregunta por cuál ha sido la actitud política y reivindicativa del lehendakari en ese foro

para estimular la producción la inversión responsable y el consumo hemos planteado el modelo de economía humanista y solidaria que en realidad siempre a caracterizado a europa

en definitiva también en relación a europa hemos propuesto un compromiso con la europa social además y en relación a la política económica y financiera a la que usted hacía referencia también

de una contrapartida a las entidades financieras para que devuelvan el esfuerzo público recibido

parte de esta ayuda a facilitar el crédito a la empresa como vía para mantener la actividad y el empleo

a las que se puede aplicar una tasa o tributación tal y como aprobó la propia comisión europea hace ya más de dos años no se trata de plantear una tasa sino de poner en marcha la tasa que ya fue aprobada y he planteado también en ese foro

del programa europeo de garantía juvenil para ofrecer un horizonte de integración

un objetivo señor prieto que tal y como he apuntado está en el centro de las preocupaciones de la unión europea y es preciso que gane terreno en el centro de sus ocupaciones

he pedido sugerido y planteado medidas pero sobre todo he comprometido las propias las de este gobierno un compromiso con las medidas de estímulo a la economía real y productiva

un compromiso señor prieto de la política económica o con la política económica también y de la política económica con el compromiso de equilibrio y cohesión social eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari miembros del gobierno buenos días

veintisiete de diciembre de dos mil trece la directora de víctimas y derechos humanos se resuelven las subvenciones a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos en materia de paz convivencia y derechos humanos esta

el pasado veinticinco de febrero de dos mil catorce vemos que tiene un número mazazo se conceden a etxerat asociación de familiares de presos de eta dos subvenciones de cerca de catorce mil euros pensamos que es un plan de

y en relación con esta subvención señor lehendakari qué clave que desconozcamos vincula a este colectivo en favor de eta

cómo ha valorado en la concesión de las subvenciones el gobierno vasco la contribución a la convivencia y a la paz

que defiende los intereses de los presos de eta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

calificador analiza las solicitudes que se presentan en función de unos criterios de valoración

y están descritos detalladamente en la propia resolución de la convocatoria señor barrio el proceso por lo tanto es transparente y está regido por el principio de concurrencia competitiva

se ha subvencionado a setenta y cuatro asociaciones diferentes la asociación de apoyo a familiares de presos etxerat presentó cuatro proyectos y el tribunal aprobó como usted bien ha dicho dos de ellos etxerat

está inscrita en el registro de asociaciones y tiene por lo tanto derecho a plantear sus proyectos en el marco de las actividades por las que se encuentra registrada

cumplen por lo tanto también con los requisitos establecidos en la convocatoria no es suficiente señor barrio con declarar el respeto a las reglas de juego es necesario practicarlo también eskerrik asko

claro que sí es transparente si eso no lo negamos transparente en favor de etxerat

de los familiares de presos de eta que no trabajan por la convivencia en este país mire

donde ha estado vinculado el propio secretario de paz y convivencia hasta hace un momento recibe tres veces más que covite por ejemplo

trabajos que pueden ser necesarios buenos para esta sociedad que van a trabajar y profundizar en la paz y en la convivencia y en los derechos humanos pero batetik por ejemplo recibe tres veces más que covite pero a lo que no hay derecho señor lehendakari es que etxerat reciba más que covite que reciba cuatro veces más

qué hace la asociación de presos de eta por la paz por la convivencia por los derechos humanos dígamelo

exija a sus familiares terroristas que pidan perdón por los crímenes cometidos o que disuelvan eta no he leído que etxerat pida a sus familiares terroristas encarcelados por crímenes que pidan perdón a las víctimas de eta no lo he oído eso sería trabajar por la convivencia por los derechos humanos y por la paz y eso no lo hace es

homenajes y acogidas a los presos de eta señor lehendakari ustedes pasan todo el rato mirando

y al entorno dichoso con los verificadores y sus favores a eta con las subvenciones anticonvivencia con las

en la cámara con las manifestaciones a favor de los presos de eta

contra el gobierno de españa día sí y día también por su parte es muy triste señor lehendakari este escoramiento radical por momentos de su gobierno manifestaciones en favor de los presos de eta conjuntamente con bildu y con sortu acogimiento a los verificadores en favor de eta

ayudas a los homenajeadores de eta señor lehendakari es increíble pero es cierto muchas gracias eskerrik asko

señor barrio reitero proceso transparente regido por el principio de concurrencia competitiva

y están descritos detalladamente en la propia resolución de la convocatoria cuánto tendremos que escuchar que estamos permanente mirando a este lado no será más que ustedes nos hacen mirar a ese lado permanentemente porque ustedes no se mueven vamos al fondo de la cuestión señor barrio

defiendo que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social lo defiendo

defiendo la necesidad de evitar que el cumplimiento de la condena origine el desarraigo familiar y social motivado por el alejamiento entre la prisión y el ámbito natural de socialización lo defiendo

defiendo por lo tanto una política penitenciaria más flexible en el marco de la legalidad

y hoy esta flexibilidad creo que es más necesaria y está más justificada que nunca la he defendido siempre el problema señor barrio es que ustedes tienen el problema que lo defendían y aplicaban hace quince dieciséis años

que vivimos en un nuevo tiempo y que ustedes son ahora los que se resisten a aplicar los preceptos de la constitución de la ley general penitenciaria y de la más elemental lógica política

y esto es lo que en todo caso la asociación etxerat en su caso defenderá no me voy a enredar con usted

ni tampoco me voy a enredar en lo que usted me critica o me denuncia de homenajes y recibimientos acogidas cuando sobre eso ya se han pronunciado también los jueces

sí gracias presidenta señora consejera le pregunto por el aeropuerto de foronda es un tema que lo debatimos aquí

una semana llegamos a un acuerdo y también se llegó a un acuerdo ese mismo día en el congreso de los diputados le pregunto por el alcance que considera usted tiene

en el congreso si piensa que va a cumplirse y si piensa en todo caso que sería un acuerdo suficiente para garantizar el futuro de foronda el acuerdo alcanzado en el congreso aparentemente parece que podría garantizar que foronda vaya a recuperar

porque de momento el único que hay es el acuerdo de abrirlo a la demanda con preaviso de cuatro horas y porque además conocemos alguna noticia

por parte del gobierno de españa a un grupo parlamentario del congreso una noticia que usted misma estaba leyendo hace escasos minutos y de cuya respuesta pues efectivamente nos hacemos eco nos preocupa porque

es que en estos momentos no se estima procedente retornar al antiguo horario operativo ya que actualmente no hay demanda de vuelos de transporte regular de pasajeros

de vitoria esta es la respuesta que recientemente daba el gobierno de españa a un grupo de la oposición qué es lo que nosotros pensamos que debería hacerse aquí a parte de

con altura de miras y observando el interés general de los ciudadanos nosotros propondríamos que foronda se convierta en un aeropuerto de referencia para el norte de españa para los vuelos de pasajeros de media y larga distancia loiu es estratégico sin duda pero tiene ciertas limitaciones

loiu aeropuerto estratégico para vuelos domésticos y de media distancia y foronda aeropuerto de referencia para los vuelos internacionales de larga distancia y para la carga pensamos que sería un modelo factible realizable y rentabilizable si se actúa eso sí con inteligencia con responsabilidad

adecuada olvidando las luchas locales y protagonismos absurdos lo que en todo caso no tiene ningún sentido es que el mejor aeropuerto y más seguro de todo el norte de españa esté prácticamente muerto a día de hoy o claramente infrautilizado por eso le preguntamos

acuerdo habido en el congreso si piensa que va a cumplirse y en el caso de que se cumpliera si piensa usted que sería suficiente en fin cómo ve usted en definitiva
el futuro de este aeropuerto tan importante eskerrik asko maneiro jauna

sí señor maneiro una precisión el acuerdo de

y los trabajadores no es el acuerdo adoptado en el congreso de los diputados el acuerdo adoptado en congreso de los diputados insta al gobierno del estado

a continuar trabajando en la mejora de la eficiencia del aeropuerto de vitoria garantizando su sostenibilidad

y usuarios que permitirán al aeropuerto a aumentar sus servicios en cualquier momento en función de la demanda de forma que no se limiten las posibilidades del desarrollo local y autonómico ese es el acuerdo del congreso de diputados un poco por puntualizar y no para nuestro gobierno para el gobierno vasco

ni la resolución aprobada en el congreso de los diputados aunque entendemos que son positivas porque toda mejora que veamos en relación a la situación actual lo vemos como positivo creemos que son insuficientes para garantizar el futuro yy por eso seguimos trabajando como he tenido ocasión

viene bastante de acuerdo con lo que usted acaba de explicar en una planificación hecha de una manera responsable y no cortoplacista

de un aeropuerto tres terminales y que espero traerá a esta cámara en breve eskerrik asko

y compartimos que efectivamente este es un acuerdo claramente insuficiente y además no nos fiamos del gobierno de españa en relación al cumplimiento ni siquiera de este acuerdo sabemos lo que ha hecho en los últimos tiempos en relación a este aeropuerto no nos fiamos en absoluto de él sabemos cómo ha actuado en los últimos tiempos ha invertido por ejemplo incomprensiblemente en los aeropuertos de zaragoza logroño o burgos en lugar de elegir foronda cuando habría sido

razonable en todo caso no valen parches ni declaraciones electoralistas ni palabras ni promesas sino hechos y más allá de aeropuerto con tres terminales yo creo que lo que habría que hacer es tener una visión global del país de españa e incluso del conjunto de europa para tomar las mejores decisiones y creo que

que foronda pudiera ser aeropuerto internacional de referencia del norte de españa creo que es lo que ustedes también deberían defender en el congreso de los diputados normalmente las personas razonables se acercan a upyd o están cercanas a upyd usted es una persona
usted es una persona razonable y creo que podríamos coincidir en muchos puntos eskerrik asko maneiro jauna

este gobierno no va a cejar de reclamar la competencia aeroportuaria como usted sabe ni de proponer como medida transitoria participar en la gestión de los mismos tal y como se refleja en el texto del estatuto de autonomía de gernika consideramos

de manera que pueda estar a disposición de los potenciales usuarios ya sean vuelos de pasajeros como de carga con plena potencialidad tal y como de hecho lo pueden hacer otros aeropuertos que efectivamente dicho de paso no disponen de las condiciones técnicas de foronda ni de sus capacidades para acoger todo tipo de trafico aéreo que sin embargo se están potenciando

en otros lugares del estado una vez más decirle

es un gran aeropuerto apostamos por foronda seguimos pidiendo participar en la gestión de foronda y no cejaremos en este empeño eskerrik asko